creo que en este asunto nuestra enmienda planteada nuestra enmienda de totalidad expresa perfectamente bien qué es lo que nosotros defendemos en este asunto y vistas las transaccionales habidas y las enmiendas planteadas por algún grupo como el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos lógicamente

al resto de grupos que se oponen al copago farmacéutico que voten también a favor de esta enmienda en el caso de que el resto de iniciativas o enmiendas no prosperen ya digo que nuestra enmienda expresa perfectamente bien qué es lo que pensamos

nuestro compromiso rotundo por el mantenimiento de un sistema de salud público universal y de calidad queremos mostrar nuestro rechazo contundente y claro

en materia sanitaria y especialmente a aquellos relacionados con el aumento de la aportación de los asegurados en el precio de los medicamentos y los que implican que los pensionistas tengan que pagar una parte del costo de los medicamentos instamos al gobierno de españa a revocar

el real decreto de medidas urgentes para garantizar se llama así la sostenibilidad del sistema nacional de salud en lo relativo al aumento del copago farmacéutico y finalmente lo que para nosotros es muy importante instamos al gobierno

la prestación sanitaria normalizada a todos los inmigrantes independientemente de su situación legal es decir queremos que los inmigrantes puedan ser atendidos pero no solamente en euskadi sino fuera de euskadi también en el conjunto de españa es lo que defendemos y lo que está planteado también por lo tanto en esa

ni una sola razón para discriminarlos y las hay todas para atenderlos como al resto de ciudadanos por lo tanto nuestra posición creo que es en contra de los recortes sociales impulsados por el gobierno central estamos también en contra y así lo hemos dicho en diferentes instituciones de sus planes

especialmente el acometido en madrid pero por ser justos también hay que decir que estamos en contra y así nos manifestamos en su momento de las políticas del señor zapatero que llevaron prácticamente a la ruina digo por ser justos también hay que recordar lo que esas políticas socialistas durante años han hecho que la situación del país la que es y desde luego los nuevos recortes sociales impulsados por este gobierno no ayudan ni van a ayudar a salir de esta situación sino más bien todo lo contrario por lo tanto

y al copago farmacéutico que es lo que debatimos en este punto lo que no vamos a hacer es avalar posiciones insumisas o ilegales o alegales o desobedientes ni vamos a avalar o proponer fondos o compensaciones o parches ni estamos de acuerdo en el sálvese quien pueda autonómico ni en la utilización de su subterfugios para no cumplir la ley

esa es la realidad de los hechos y en absoluto estamos de acuerdo con lo que plantean en esa enmienda transada

y el grupo socialista y especialmente en sus puntos tres y cuatro no vamos a apoyar instar al gobierno vasco a la creación de un fondo económico de compensación

del cupo las cantidades correspondientes a las compensaciones efectuadas nos parece un verdadero disparate no lo avalamos no estamos de acuerdo con esa forma de proceder

finalmente nuestra enmienda de totalidad votaremos a favor de ella y pido al resto de grupos que en caso de que no salgan adelante el resto de enmiendas todos aquellos que estén en contra del copago todos aquellos que estén en contra de estos recortes sociales

a favor de nuestra enmienda de totalidad muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den

berriro egun on legebiltzarkideok las dos iniciativas presentadas por psoe y eh bildu muestran su rechazo a las medidas contempladas en el real decreto

urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones e instan al gobierno vasco

se ha llegado a un acuerdo al que obviamente luego me voy a referir porque no puede pasar desapercibido la actual situación de crisis económica ha dejado en evidencia las debilidades

millónes de deuda que arrastra el sistema que ha puesto en riesgo el sistema sanitario público que tenemos ongizate sistema aurrera

mantenduz el partido popular quiere blindar la sanidad pública de los efectos de la crisis económica para que siga siendo

y porque sabemos que en españa tenemos uno de los mejores sistemas de salud y como ustedes comprenderán señorías queremos mantenerlo y asegurar su futuro las comunidades autónomas sean del color que sean han venido solicitando de forma reiterada la articulación de un sistema de financiación que otorgue estabilidad a nuestra sanidad

es en los momentos de especiales dificultades como el que estamos atravesando

que los gobiernos tomen decisiones porque señorías no se puede mirar para otro lado como aquí ha hecho el gobierno de españa

durante tantos años desgraciadamente si se hubieran hecho

hubieran tomado ciertas medidas desde luego no hubiéramos estado en la situación en la que estamos y se encontró el partido popular

de españa las medidas adoptadas se encuadran en un ambicioso plan de reformas que garantiza la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema

la confianza en nuestros pacientes las medidas que se contemplan garantizan el actual modelo sanitario recogido en la ley general de sanidad no hay cambio de modelo señorías y mejora los procedimientos para el acceso a la asistencia sanitaria evitando incertidumbres inseguradidades y abusos que también los había

para evitar el descontrol que suponía que cualquier persona sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de empadronarse en nuestro país

tuviese derecho a la tarjeta sanitaria la tarjeta sanitaria

entre otras cosas que hubiera personas que viajaban a nuestro país a sacarse la tarjeta sanitaria por el mero hecho de estar empadronadas volviesen al suyo se operasen y la sanidad española se hiciera cargo de esa operación y de la posible atención

la tarjeta sanitaria confiere derechos de atención sanitaria de cara al futuro y no solo

es una reforma que garantiza la universalidad y evita el turismo sanitario ninguna persona que lo necesite va a quedar desatendida sea española o de otra nacionalidad pero se evita desde luego que por lagunas

puedan beneficiarse de forma gratuita algunas personas de los servicios sanitarios españoles señorías es que se producían abusos

una más al no ver adaptado a la legislación española debidamente la normativa comunitaria esta dejación de los anteriores gobiernos socialistas abrió la puerta a los abusos del llamado turismo sanitario que ha ocasionado gastos indebidos a nuestro sistema

en un solo ejercicio en el año dos mil nueve como ha puesto de manifiesto el tribunal de cuentas el sistema sanitario español estaba asumiendo indebidamente con cargo a nuestros presupuestos la asistencia sanitaria de personas que ya la tenían cubierta en sus países de origen

se debería de dar gracias obviamente al gobierno socialista solo en el año dos mil nueve nuestro país

a otros países por la asistencia sanitaria a más

ciudadanos se dice pronto por tanto

y directa como tiene que ser a los países de origen cuando personas de otra nacionalidad sean atendidas en nuestro sistema de salud como nos pasa a nosotros cuando vamos a otros países

y de la unión europea mediante este decreto ley todos los españoles tienen garantizado el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria estableciendo un único

puede encontrarse el avance es la universalización

pública los ciudadanos de otras nacionalidades que no tengan residencia en españa ya porque sean turistas ya sea porque residen de forma irregular en españa no van a quedar desatendidos la nueva normativa asegura que recibirán siempre asistencia sanitaria en casos de urgencia

hasta la situación de alta medica además recibirán los cuidados en caso de embarazo parto

y también se garantiza de forma mucho más generosa que en ninguno de los países de la unión europea la asistencia a los menores de edad en todos los casos y en igualdad que los españoles menores de edad ningún otro país europeo ofrece una cobertura asistencial tan amplia a los extranjeros

irregular ninguno señorías en cuanto a los turistas comunitarios se facturara la asistencia a su país a través de la tarjeta sanitaria europea

no pasaba como hacemos los españoles cuando vamos a cualquier país europeo si no la tienen

o aplicando lo que establecen los respectivos convenios bilaterales entre los países

además se atenderá los casos de ayuda humanitaria con convenios similares a los que se utilizan por ejemplo

niños enfermos en países de desarrollo y ustedes saben también que existen programas de prevención y control de enfermedades infecciosas prevalentes como

no generen una alarma innecesaria es evidente que desde hace tiempo nuestro sistema de salud

y eso a pesar de que el gasto farmacéutico representa más del veintidós por ciento del total del gasto sanitario

es uno de los mayores consumidores de medicamentos así se acumulan cerca de tres mil setecientos setenta toneladas de envases que suponen

generaba injusticias como el hecho de que los parados sin prestación tenían que abonar el cuarenta por ciento de sus medicamentos

insisto nuevo copago farmacéutico que ya existía porque aquí se pagaban las medicinas y no es un copago sanitario que sé es precisamente lo que hay en la mayoría de los países

se ha buscado una forma más justa y equitativa estableciendo nuevos criterios como la renta edad o grado de enfermedad así aportan más los que más tienen y los que menos tienen no aportan nada o aportan menos a la vez que como decía antes se han incorporado nuevos colectivos exentos de aportación

el cuarenta por ciento de los medicamentos que pagaban antes con el gobierno del señor

se mantiene la diferencia entre activos y pensionistas y se establecen también tramos en función de la renta se ha establecido la prescripción de las dosis adecuadas a cada tratamiento es que esto antes no pasaba y esto es lo que pasaba en la mayoría de los países en la unión europea aquí zapatero por desmarcarse pues hacíamos totalmente lo contrario a lo que parece

de nuestro alrededor el decreto ley también aborda la cartera básica sanitaria

de servicios común para garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones así se va a garantizar se garantiza que todos los ciudadanos tengan los mismos derecho y el acceso a las mismas prestaciones

no entendemos como upyd se posiciona en contra de todas estas cuestiones aprovecho para recordar aquí que somos el país de la unión europea que a pesar de la crisis mantiene gratuita una cartera asistencial tan amplia el gobierno del partido popular de calado voy acabando señora presidenta del sistema nacional de salud garantizando el modelo sanitario español y sin establecer ningún tipo de copago en la asistencia sanitaria señorías repito no se va a cobrar por la asistencia sanitaria como por cierto sucede en la mayoría de los países de europa van a seguir siendo gratuitos los servicios de prevención

que se dispensan en centros sanitarios todas estas medidas sin duda hacen el sistema más solidario más equitativo y más justo tengan por seguro

está actuando con absoluta responsabilidad velando por el interés de todos los ciudadanos y en especial por aquellos que más están sufriendo la crisis como son los parados

los pensionistas sí señora roncal los pensionistas aquellos a los que el partido socialista congeló las pensiones

y en general las personas que carecen de recursos por todo lo expuesto y como entendemos que se ha emprendido el camino correcto animamos al gobierno del partido popular a seguir haciendo las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud

y el partido socialista que últimamente parece que acuerdan muchas cosas y desde luego me parece ya esto un auténtico salto al vacío esto ya no son contradicciones esto ya son saltos al vacío dicen que no pagamos y que además nos los paguen los demás vienen a decir que se descuente del cupo lo que

no es lícito que el modelo de bienestar desarrollada con tanto esfuerzo en euskadi se vea perjudicada por un real decreto ley

y que encima no se ha negociado ni consensuado con nuestros representantes institucionales

compartimos algunos argumentos que han señalado aquí algunos grupos aunque no del todo y desde luego lo que no compartimos en absoluto son los que ha dicho

pp se ha dedicado casi todo su tiempo

el decreto dieciséis barra dos mil doce decreto de recortes por antonomasia recortes de derechos ya sabemos que tiene por obligación que defenderlo

hablándonos de la bondad de semejante decreto y todo

pero claro tiene mucha gracia esa defensa de la sostenibilidad cuando recurren contra un proyecto puesto en marcha por el sistema andaluz de salud que es la subasta de medicamentos que abarata muchísimo la factura de la farmacia

que una vez más se han pasado por otro lado también tengo que recordarle que no hace mucho hemos vuelto a debatir en esa cámara sobre el copago

en representación de su grupo político se opuso como el resto de la cámara

el colmo de la ridiculez que por lo visto zapatero ha debido de ser el médico de toda españa que ha recetado una serie de medicamentos carísimos

arruinar la comunidad de valencia la de murcia y otras tantas y por eso necesitan rescate y no pagan a sus proveedores es culpa de zapatero todo ya sabemos que ha sido el médico de españa por favor señora garrido

a defender con unos argumentos absolutamente rechazables

que comparto prácticamente todo los argumentos que ha presentado aquí

que rechazar el copago aun atendiendo al auto del tribunal constitucional mediante la creación de un fondo que compense lo repagado por los ciudadanos no significa ampliar el presupuesto sanitario que ya sabemos que hay dificultades

es un fondo que los ciudadanos pagan de más y que lo único que se pide es que se les devuelva por la otra mano el mismo dinero

que se le devuelva no significa incremento de presupuesto sanitario significa

por tanto y además vuelvo a insistir en que tenemos capacidad competencias recursos económicos y creo que

reflexionaran a cerca de qué significa eso y que modularan y realizaran una propuesta de cómo se podría gestionar ese fondo

sí señora roncal o poca memoria o poco rigor a la hora de llevar los temas

nos hemos opuesto al copago sanitario pero es que aquí no se ha establecido ningún tipo de copago sanitario se han establecido nuevos criterios en el copago farmaceútico que es que ya había copago farmaceútico es que ya pagábamos las medicinas

antes los parados de larga duración pagaban el cuarenta por ciento ahora con la reforma del partido popular y con las medidas del partido popular están exentos los parados de larga duración

imagino que también le parecerá más justo que con el gobierno de zapatero todos los pensionistas pagaran igual independientemente de la renta pues ahora no

de aportación en función de la renta también en los pensionistas me imagino que todo eso le parecerá más justo por lo tanto ya le digo que no sé si poco rigor o

socialista entiendo que tampoco se pueda desmarcar mire copago sanitario

hay en otros sitios de españa copago sanitario por la atención primaria por la atención especializada o por pruebas diagnósticas

se paga tres coma sesenta y tres euros por episodio de enfermedad en cada trimestre en finlandia pago máximo de once euros tres primeras visitas en el año o contribución anual de un máximo de veintidós euros

pero es que esto no hay en españa señora roncal mire la atención especializada en alemania

trimestre esto sí que es copago sanitario y pago máximo

estos sí que son copagos sanitarios lo que hay en otros países de la unión europea y con el gasto farmaceútico

aquí no haber aplicado las medidas contempladas en este real decreto y el señor

decreto en ese momento estaba queriendo hacer de la forma que fuese posible oposición al gobierno de mariano rajoy y para eso utilizó

el cargo de lehendakari imagino que por eso también perdieron los escaños

donde el ahorro farmaceútico ha descendido menos de toda españa euskadi ahorra cuarenta y tres millónes en recetas el menor descenso de toda españa

el nuevo copago farmaceútico porque ya había copago farmaceútico tiene un claro efecto

imagino que habrá tenido ocasión al ver los datos y mire con la tarjeta sanitaria

con el empadronamiento al cruzar los datos de cuarenta y cinco millónes de recetas individuales se han constatado situaciones irregulares

de otra persona cuando en realidad estaban dados de alta en la seguridad social

accedían a la sanidad como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos y de las quinientos cincuenta y dos mil tarjetas de personas sin recursos quinientos treinta mil tenían recursos

euros anuales no sé si esto usted lo considera fraude a ustedes que tanto les gusta hablar de fraude si esto es fraude

en relación al tribunal constitucional usted debería también de saber

y que desde luego no entra en el fondo del asunto también me imagino que eso lo sabrá mire aquí el doble discurso del partido socialista es que ya nos lo sabemos demasiado

en contra de la gestión privada porque la titularidad sigue siendo pública de la sanidad madrileña y cuando en andalucía uno de cada tres hospitales solo es público

o digo eso de donde digo dije lo que dije y ahora digo otra cosa porque

aquel que se realiza para garantizar el uso racional de los servicios cobrando una pequeña cantidad de dinero de los ciudadanos cada vez que acuden a la consulta del médico serviría para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud eso lo dijo la que fue ministra de sanidad en diciembre de dos mil diez

con el partido socialista decía que estaba estudiando establecer el copago de los servicios sanitarios es que aquí hablaba del copago de servicios sanitarios directamente por parte de los ciudadanos

carlos ocaña secretario de estado de hacienda del partido socialista también con grandes responsabilidades en el partido socialista en el gobierno el copago ahora es posible también nos decía eso y alguien que tampoco está muy lejos como es ramón jáuregui

incorporar copagos en sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada por eso que donde dije una cosa ahora digo la contraria y ya decía anteriormente que

no es una mera contradicción no es una incoherencia no son demagogias no es que uno hace una cosa y hace otra y

ya propugnan de la mano de eh bildu directamente la desobediencia y dicen que

que nosotros no tenemos que pagar solo le ha faltado decir que porque nosotros lo valemos

sea al final aplicar el copago y que entienda que no hay otro margen

que se han adoptado y que son de aplicación en todas las comunidades autónomas que es la legislación básica

la opción de incumplir de forma unilateral con nuestras obligaciones si nosotros incumplimos el pacto puede que la otra parte aproveche para que incumpla las suyas beno lehendakari

señora presidenta no hemos entendido en qué consistía qué enmienda era la que estábamos votando
hay dos enmiendas

gracias señora presidenta buenos días a todos la verdad es que este tema

de los últimos de la anterior legislatura y debemos por desgracia empezar

en parecidos términos en esta legislatura la justicia gratuita como medio para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo veinticuatro

necesita de recursos y de una regulación adecuada

los de los letrados que prestan el servicio y el propio sistema judicial el pasado uno de septiembre sin acuerdos sin conversaciones que fructificasen entró en vigor el nuevo decreto

tras más de tres años de infructuosas negociaciones entre el departamento de justicia y los colegios de abodagos que como digo

decreto que ha desmontado un servicio que funcionaba bien y al que se destinaban unos recursos

mucho se ha debatido en esta cámara sobre este decreto y sobre la procedencia de él mismo como dijimos

a pesar de la complejidad de muchos asuntos efectivamente el servicio funcionaba correctamente y tanto los profesionales como los usuarios estaban razonablemente satisfechos siendo el número de quejas muy pequeño en comparación con el volumen

a pesar de este correcto funcionamiento como decia desde el principio de la anterior legislatura el departamento de justicia dejó clara la empecinada intención de modificar el decreto

son profesionales independientes y no funcionarios con la justificación de hacer un uso transparente de los fondos públicos como si hasta ese momento

la intención de modificar la ley de justicia gratuita ley que tras más de quince años de vigencia y ante una muy diferente situación socioeconómica y jurídica es cierto que debe ser reformada

el actual gobierno del partido popular sí tiene ya un anteproyecto de ley de justicia gratuita

ya se puso de manifiesto que dada la ausencia de quejas y de problemas del anterior decreto regulador de la justicia gratuita en el país vasco era procedente esperar a la nueva ley y después plantease la adaptación de nuestro decreto a la misma

si se empecinaba en realizar el anterior departamento cambios en nuestra regulación el objetivo debiera de haber sido mejorar el servicio y su calidad y evidentemente no lo contrario que es lo que se venía denunciando lo que iba a ocurrir y lo que finalmente ha sucedido

además la modificación debería de haberse hecho de acuerdo con aquellos que van a gestionar y prestar el servicio con los profesionales con los colegios de abogados cosa que tampoco ha sucedido los colegios de abogados

en la negociación del decreto velaron por los derechos de los profesionales y por el correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita para todos los vascos

estaban defendiendo sus intereses el borrador de decreto que se presentó para las negociaciones era un glosario de eficiencias se inmiscuía en el funcionamiento de los colegios profesionales y aumentaba la burocratización establecía una obligación en el profesional de perseguir a los solicitantes para que tramitasen la justicia gratuita

la que debe de responsabilizarse de la comprobación de la insuficiencia de recursos por parte del beneficiario organizaba de forma incorrecta la asignación de letrados de guardia

y modificaba los módulos de compensación entre otras cosas ante esto los colegios de abogados mostraron discrepancias con el decreto desde el principio desde su planteamiento dejando patente las disfunciones materiales y de fondo así como formales de la nueva regulación planteada

por lo que a propuesta de este grupo esta cámara se pronunció el diecisiete de octubre del dos mil once

un consenso sustancial en torno al nuevo decreto previo la aprobación del mismo

pero como hemos dicho en muchas ocasiones lo que se pretendía

era abrir una vía de entendimiento para corregir y en su caso eliminar esas disfunciones que ya he dicho contenía el borrador y procurar que las modificaciones se hiciesen teniendo en cuenta la opinión

servicio de justicia gratuita pero las actuaciones del anterior departamento en este asunto estuvieron totalmente

si se hubiese querido llegar a algún tipo de acuerdo no hubo ninguna intención de llegar a este acuerdo ninguna intención de negociar ni siquiera se contestaron a las cuarenta y cinco páginas de alegaciones presentadas por el consejo vasco de la abogacía hubo fue intención de obviar los mandatos de esta cámara incluso se llegó a advertir de la creación de una oficina de turno de oficio se desechó probablemente porque la complejidad y el costo como ya hemos dicho aquí en alguna ocasión hubiese sido mucho mayores ya que hubiesen tenido que dar medios materiales y medios personales que desde luego se hubiesen llevado muchos más fondos públicos

de los colegios de abogados y que se pusieron de manifiesto en esta cámara han quedado patentes

es ahora ya no una advertencia sino una realidad no beneficia a nadie

ni a los usuarios del mismo ni al propio servicio en el tiempo que lleva en vigor se ha puesto de manifiesto que puede incluso haber casos de indefensión ya que las designaciones

no procedía ya sabemos que la justicia tardía es menos justicia

legislación por ello en primer término es necesario una simplificación de los trámites que el actual decreto contiene la exposición de motivos del decreto

cuando señala que la regulación clarifica las funciones más bien al contrario

muy complicados tanto para el beneficiario de justicia gratuita como para los propios profesionales y además el decreto provoca que el letrado más que de la defensa tenga que ocuparse de los tramites de petición de justicia gratuita a actuar más como administrativos que como abogados les obliga a estar más pendiente de un expediente administrativo quitándole tiempo y esfuerzo

también es necesario que se regule de forma distinta la prevista en el actual decreto el número de letrados de guardia el control de la gestión del servicio no debe corresponder al gobierno vasco ya que no le compete

realizando con absoluta transparencia y eficacia lo adecuado es que sean los propios colegios en coordinación con los órganos judiciales

en función de las necesidades y de la carga de cada uno de ellos con el nuevo decreto

son los que sufragan parte de la organización de este servicio ya que por parte del gobierno vasco no se abona la integridad de todos los costes administrativos que conlleva la gestión de la asistencia jurídica gratuita es decir

otra de las disfunciones del decreto es el cobro de los honorarios por parte de los letrados

pareciera que el anterior gobierno pretendiese garantizar el derecho de justicia gratuita a costa de no pagar a los abogados por tanto los colegios de abogados lo que solicitaban y siguen solicitando es una solución a los llamados casos fallidos es que independientemente de lo que haga su defendido en la tramitación del beneficio de justicia gratuita

si trabaja deba cobrar si finalmente no se tiene derecho al beneficio de justicia gratuita porque nosotros estamos de acuerdo que solo aquellos

la administración reclamará al justiciable pero lo que no debe suceder

como digo el letrado trabaje sin que su labor se vea remunerada en el borrador del proyecto de ley de justicia gratuita así se contempla que los profesionales cobren en todo caso sin perjuicio de que se pueda repetir contra quien finalmente no le correspondiese ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita este es uno de los principales problemas que provoca el decreto para los letrados que componen el turno de oficio y que provocó que anunciase una huelga

y se amenazase con dejar de turnar a partir del pasado quince de enero como ya hemos dicho

en ley podría suponer la derogación de facto de más de la mitad del articulado de este decreto por ello

acabar con todos aquellos problemas que el nuevo decreto ha dado

se proceda en su caso a las modificaciones que procedan a fin de adaptarse a la nueva ley y de mejorar el servicio

aunque es cierto que no se ha formalizado la demanda en la sala de lo contencioso administrativo finalmente no se ha hecho así porque los colegios han querido dar muestras de voluntad de acuerdo y de llegar a entendimientos

es lo que hemos pretendido con la enmienda transaccional que hemos firmado finalmente con el partido nacionalista vasco dar un voto de confianza al nuevo gobierno que se ha mostrado

a eliminar todas estas disfunciones que el decreto ha provocado y a resolver todos los problemas que como digo dicho decreto ha traído y es nuestro grupo lo que solicita es que por parte del gobierno se aproveche este margen de confianza que si finalmente

resulta aprobada no se haga como con anteriores mandatos de este parlamento que se obviaron totalmente y que desde luego no se cumplieron como así se establecía nosotros solicitamos de este gobierno que aproveche este margen de confianza que no defraude ni las expectativas tanto de este grupo como por parte de los propios profesionales que sí

de confianza que finalmente se lleven a cabo todas las medidas que fuesen pertinentes para acabar con las disfunciones para garantizar los derechos

y de los servicios y órganos que lo prestan esperamos de verdad que este servicio funcione correctamente y que en su día cuando se apruebe la ley

sin más solicitar el apoyo para esta enmienda nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda

bueno vamos a ver efectivamente es cierto que esto ya se ha debatido en multitud de ocasiones no es la primera vez y por eso

una intervención que seguro les sonará porque como digo esto ya se debatió

que las que mantuvo entonces es decir vamos a defender lo mismo

vamos a mantener el mismo criterio como digo y ese criterio no es otro que el de apostar y considerar necesario

porque logra los objetivos que defendía señora llanos ha dotado de mayor control transparencia y agilización a la gestión del servicio ha ampliado los supuestos de reconocimiento de derecho y los módulos establece esto es una apuesta personal del grupo socialista del partido socialista la elección de abogado con limitación de llamamientos

de asistencia al detenido ha agilizado los pagos a los letrados y ha habilitado previamente

y los turnos de guardia etcétera y yo y usted también

que soy abogada en ejercicio colegiada en gipuzkoa y que llevo veintiséis años adscrita al turno de oficio y al servicio de asistencia jurídica

sobre todo en los últimos las condiciones económicas y de funcionamiento del servicio han cambiado y han mejorado como del negro al blanco

creo en la justicia como un valor ético como valor filosófico entendida como algo que es esencialmente bueno un valor de la sociedad

a obtener eso de lo que tanto se habla y que seguiremos hablando después que se llama tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales para ejercer sus derechos

creo en el derecho de esas personas que carecen de medios o no tienen suficientes recursos para litigar a la gratuidad de la justicia recogido también en el artículo ciento diecinueve de la constitución

a todas las personas con independencia de sus capacidades económicas creo en una justicia social igual para todos ricos o pobres

ciudadanos desprotegidos para acceder a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad creo en eso que llamamos justicia creo que en eso que llamamos el derecho a los beneficios de la justicia gratuita porque

porque eso soluciona fundamentalmente los problemas y eso que llamamos el estado de derecho no es otra cosa que la garantía que tenemos todos de que tenemos las herramientas y los mecanismos necesarios para resolver nuestros conflictos nuestros problemas

lo que nos corresponde y fundamentalmente y finalmente y además también

a cobrar por el trabajo que realizan mediante su adscripción voluntaria al servicio de justicia gratuita faltaría más en todo esto creemos

pero usted cree en la justicia como un derecho como un servicio público o cree en la justicia como un servicio privado al que pueden acceder

que pueden pagarlo cada vez menos por cierto y este servicio público en el que no creen cómo se paga se paga con fondos públicos con el dinero de todos más de unos que de otros también hay que decirlo

ese derecho en el que usted parece que no cree señora llanos por ley

esa ley a la que usted se ha referido y es una ley que determina textualmente

la asistencia la representación no solo abogados también procuradores etcétera solo puede ser pagada con nuestro dinerito con el dinerito de todos

del derecho a la asistencia gratuita en los términos previstos por la ley esa ley dicho sea de paso señora llanos que ustedes cumplen

allí donde gobiernan donde además de no pagar ni un solo duro

justicia gratuita abonan cantidades insultantes por ridículas en los turnos de guardia y le voy a poner un ejemplo una abogada gallega

en concepto de guardias de asistencia al detenido al trimestre aquí yo no sé ustedes en bizkaia pero aquí yo en gipuzkoa

de guardia solo por ese concepto en euskadi se pagan casi tres millónes trescientos diez mil de euros

no hay comunidad autónoma en este país que retribuya ni de lejos lo que se paga aquí

qué podemos decir donde se han aumentado no solamente la cuantía de los módulos se han aumentado

todas esas segundas instancias que antes no entraban esas actuaciones en el orden social que tampoco antes entraban incluso juicios de faltas en determinadas condiciones cuando no

la presencia de letrado efectivamente el único punto de fricción ha sido el tema

de los fallidos y el problema ha sido fundamentalmente

voy a decir claramente que mi opinión es que

a encontrar soluciones a esos supuestos de hecho y actuaciones procesales que no pueden solventarse por la normativa de la

estricto de legalidad no son justicia gratuita eso que dice la ley de reconocimiento expreso esa ley de la que usted habla y esa ley que ustedes aplican como decía antes a machamartillo en todas las comunidades donde gobiernan

negociaciones en aproximadamente trescientos anuales esas negociaciones de las que usted habla también había otra parte de la negociación es decir la posibilidad

probablemente se dotara a los colegios de un monto aproximadamente del dos coma cinco por ciento de una

es el turno de oficio y la justicia gratuita más de siete millónes de euros al año

a razón de trescientos casos fallidos más o menos al año estamos hablando de quinientos treinta y ocho euros por fallido

de abogados ya hablamos anteriormente también de la disponibilidad yo creo que la disponibilidad en fin cuando dos personas o dos grupos o dos

discuten sobre algo e intentan llegar a un acuerdo la disponibilidad para el acuerdo tiene que ser mutua

quien tiene que demostrar que no se ha podido llegar a un acuerdo por falta de interés el gobierno

planificar un decreto que no clarificaba muchas cosas

se atendía a determinadas personas y que lo pagamos todos como digo y como decía antes

vamos a ser serios el decreto de justicia gratuita no tiene como fin exclusivo que es lo que parece garantizar el derecho de los abogados al cobro tiene que garantizarlo y de hecho usted sabe exactamente igual que yo

la declaración de insolvencia vía judicial exactamente igual que ahora igual que antes los abogados tenían que ir

pero el turno de oficio la justicia gratuita lo que tiene que garantizar no es solo el cobro de los abogados

de manera en fin tiene que garantizar sobre todo y asegurar que aquellos ciudadanos que no tienen dinero

y no tienen libre acceso a la jurisdicción y a la defensa de sus intereses en igualdad de condiciones lo tengan

del beneficio de justicia gratuita no es otra cosa que un derecho fundamental para terminar se me está acabando el tiempo pero sí quiero

a la enmienda transaccional la enmienda transaccional nosotros vamos a abstenernos fundamentalmente porque en cualquier caso cualquier gobierno que sea que vaya a gestionar un servicio con transparencia

con claridad con voluntad de servicio público va a tener nuestro apoyo desconocemos cuáles son las disfuncionalidades exactas

esto no sea un problema en ese caso cualquiera que sea la situación como digo

que sea sea el que sea acceda a tramitar las cosas con transparencia legalidad con claridad meridiana el grupo socialista estará ahí

eta jarriko direla no es la primera vez como se decía pero espero que sea la última que en sede parlamentaria hablamos sobre

aprobado por el gobierno socialista yo creo que este

para ilustrar aquello que en ningún caso y bajo ningún concepto se debe hacer pues el decreto

allí donde no los había a estas alturas todos conocemos cuáles son los problemas surgidos los ha expuesto la señora llanos y no me voy a volver a repetir en los mismos también es conocido que a pesar de lo reiterados mandatos de este parlamento instando

a alcanzar acuerdos con el colegio de abogados pues es evidente que también el gobierno hizo caso omiso y es intención de este gobierno

trabajar conjuntamente con los colegios de abogados para ver qué problemas reales plantea la aplicación del decreto y poder llevar a acabo las oportunas modificaciones del mismo modificaciones que habrá que hacer para superar las dificultades que se vayan detectando

en que un nuevo gobierno no puede en un plazo de quince días quitar de plano la razón al gobierno anterior y derogar el decreto

creo que eso no sería ni sensato ni prudente y además entendemos que el derogar en estos momentos el decreto crearía si cabe mayores problemas y dificultades

hasta que no se apruebe el nuevo decreto porque todos sabemos que la derogación de una norma no supone sin más de facto la entrada en vigor anteriormente vigente el nuevo decreto tendría que ser informado por la cojua y no nos quitaría por lo menos un plazo de seis meses es evidente que hay cuestiones que corregir y el gobierno tiene esa voluntad es más

comprometido públicamente a corregir las disfuncionalidades producidas conciliando el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y los legítimos intereses de los profesionales que prestan el servicio

y yo creo que es un avance muy importante y debemos ponerlo en valor además existe otra circunstancia que ya

llanos y es que todos conocemos que el ante proyecto de la ley del estado de justicia gratuita y según la información de la que dispongo está en un estado de tramitación muy avanzado y parece ser que para el verano pueda estar aprobada la ley y claro esa circunstancia nos

y nos obligará quizá a hacer cambios en el decreto tal y como ha anunciado la señora llanos hemos alcanzado un acuerdo queremos mostrar nuestra

acuerdo alcanzado invitar al resto de los grupos a que se sumen al mismo creemos que es un paso muy importante

de la solución al conflicto y la señora llanos

apelaba al gobierno ha querido aprovechar

otorga el parlamento reitero es voluntad manifiesta gobierno solucionar aquellos problemas que se vayan detectando y no tenga la menor duda de que el gobierno
no le va a defraudar eskerrik asko eskerrik asko

el proceso de redacción y aprobación del decreto ciento diez barra dos mil doce fue un despropósito en las formas y en el fondo

el proceso en los colegios de abogados que denunciaron actitudes autoritarias y prepotentes

de aquellos polvos estos lodos según el anterior decreto

uno barra mil novecientos noventa y seis eran los colegios de abogados o a través de los servicios de orientación jurídica

derecho a acogerse a este sistema y funcionaba la comisión de justicia gratuita

las concesiones de gratuidad o no que realizaba el soj de los colegios y funcionaba proveían

en la asistencia así como aquellos gastos de organización y funcionaba sin embargo el método impuesto por este nuevo decreto consiste en que sea el abogado

la solicitud de derecho de justicia gratuita cuando un abogado va a realizar la asistencia a un detenido

económica para saber si puede ser titular de los derechos de justicia gratuita

solicite debe tramitarlos en vez de lo que es urgente e importante es decir la asistencia letrada inmediata se dedica a la burocracia cuál es el cometido del abogado de oficio

o la inspección fiscal de sus bienes este decreto ignora los cometidos de cada actor perjudicando directamente al justiciable el problema está

vendrá después de que el letrado haya ejercido su asistencia después de realizado su trabajo es el conocido como los asuntos fallidos sobre los cuales ya se ha comentado y por el cual el letrado que ha llevado a cabo su trabajo deberá solicitar o en su caso emprender las acciones oportunas para cobrar el trabajo realizado

el trabajo de verificar el derecho a la justicia gratuita debe ser satisfecho por el gobierno quien habrá de haberse asegurado de que las personas que accede

los requisitos para ello por ser la administración la que cuenta con los medios suficientes eso es precisamente lo que eh bildu no parece complicado a quién le suena aquello de las nuevas tecnologías la coordinación entre las administraciones para qué tanto

se puede acceder en las haciendas forales a toda la información que se le requiere a los solicitantes de justicia gratuita el efecto práctico del actual decreto es que ha desbordado

los servicios de orientación jurídica de los colegios la saturación es insoportable las colas interminables la disfunción evidente

que han realizado ya su labor vista la situación los colegios anuncian medidas de protesta

hay propuestas de huelga entre los propios letrados y letradas acreditadas en dichos turnos si no se corrigen las disfunciones que el presente decreto genera

simplemente abogados conocedores de las leyes y nuestro trabajo no es otro que conseguir que las personas que no podían permitírselo cuenten con un profesional de garantía

de sus derechos e intereses no somos prosiguen recaudadores de impuestos ni meros dependientes de la consejería de turno de esta manera la anterior consejería de justicia deja un enfrentamiento no solo

que hoy precisamente se manifestaran en las calles de bilbo tras una pancarta que defiende la justicia gratuita se posicionó también la consejería anterior frente a una ciudadanía que utilizaba un servicio que funcionaba de forma adecuada y que posibilitaba

un servicio al que la situación de crisis aboca además cada vez a más y más ciudadanos y ciudadanas y al que habrá que dar efectividad de nuevo

es por eso que en la línea con lo que planteaban los colegios y los profesionales del derecho veíamos con buenos ojos el planteamiento de que se derogue

y que la consejería de administraciones públicas y justicia redactase un decreto en los parámetros de aquel de mil novecientos noventa y seis que mostraba al menos más efectividad más capacidad de responder a los problemas

de la nueva transacción planteada y de que la nueva consejería muestre su mayor capacidad de reacción para buscar una pronta solución en un ámbito en el que se ha instalado el conflicto

a de ser un derecho fundamental los poderes públicos en este caso la consejería de administraciones públicas y justicia han de ser los garantes de que las personas sin recursos suficientes

gracias de nuevo señora presidenta realmente

casi todo está dicho y casi todo reiterado nosotros es verdad proponíamos en una primera instancia la derogación del decreto que

se podría establecer la entrada en vigor del anterior o también es cierto como se ha dicho aquí podría

otro nuevo que evidentemente tendría pues unos plazos más largos también es cierto que tanto uno como otro en su caso se verán afectados por esa futura ley de justicia gratuita que quizás para cuando entrase en vigor este nuevo decreto pues se vería modificada porque ya entraría

este grupo no ha intentado hacer partidismo con este tema ni tan siquiera es una contestación

planteado varias veces reiteradamente en esta cámara tanto por compañeros del grupo parlamentario popular como por mí misma y

no es un uso partidista y sí como digo una reivindicación continuada porque yo de verdad

señora gallastegui el empecinamiento de su grupo en este tema es absolutamente digno de analizarse

la realidad dijeron en

es verdad que el servicio funcionaba razonablemente bien pero que se pretendía que funcionase mejor pues oiga se han dado de bruces de verdad

con esa intención porque lo que se venía diciendo que iba a funcionar peor

y absoluta y yo no entiendo claro igual es que aquí los únicos acertados son el partido socialista dueños sacrosantos de la realidad

como la perfección absoluta porque el resto los grupos políticos de esta cámara los propios profesionales

lo dijeron cuando les presentaron el borrador lo dijeron durante la negociación lo dijeron justo antes de la aprobación y lo dijeron ahora lo han dicho después de la entrada en vigor del decreto se lo han dicho

una serie de notas de todas las disfunciones del decreto que por cierto eran las que ellos ya anunciaban luego que este decreto es estupendo que viene a mejorar el servicio de justicia gratuita créanme solo lo ve el grupo socialista

piensan ustedes que son poseedores de una verdad sacrosanta pues a lo mejor es que todos los demás estamos equivocados y ustedes son los únicos acertados y por cierto he hablado de negociación y ustedes dicen que es que no ha habido voluntad de negociación mire no les voy a reiterar lo que les dije

ocasiones a propósito de este tema ustedes tienen un concepto también muy particular de lo que es una negociación un concepto muy particular porque llamar interés de negociar cuando se les hace una llamada a los colegios de abogados y se les da cita para cuatro días

esa es la idea de negociación pero es que al margen de eso que es

desde el punto de vista de fondo en una de las negociaciones les plantean ustedes según se sientan este es el nuevo borrador del decreto

una forma muy curiosa de querer negociar en la siguiente reunión les dicen ustedes vamos a crear una oficina de turno de oficio ustedes comprenderán que ante eso los letrados digan pues si van ustedes a crear una oficina de turno de oficio nosotros poco pintamos claro ya lo he dicho en mi primera intervención

para los fondos públicos desecharon la idea inmediatamente

temas que le tengo que decir es que en este momento los abogados los colegiados están pagando parte del servicio de justicia gratuita los que están en el turno y los que no por qué

no llega para la organización de la gestión del servicio no llega y eso se está sufragando la parte que no llega se está sufragando con el dinero de los colegiados y lo pagan los propios colegiados que lo pagan dos veces

y dos a través de los derechos que tienen que pagar al colegio de abogados

usted hace una serie de afirmaciones maximalistas su enmienda es como le dije la otra vez pájaros y flores

esas loas como la primera parte de su intervención y además no solamente hace eso

en la asistencia jurídica gratuita y no creemos en el derecho de todos a la tutela judicial efectiva mire nosotros sí creemos en el servicio por supuesto que creemos y queremos que funcione

correctamente y desde luego con este decreto no funciona porque eso del acceso vamos solamente para entender el decreto no lo entienden ni los propios profesionales del derecho con lo cual el ciudadano medio difícil
y eso llanos andrea amaitzen joan mesedez voy finalizando señora presidenta

en garantizar el acceso de todos que el servicio funcione correctamente y ello supone que se tengan en cuenta las consideraciones de quien es como he dicho un puntal

que es los colegios de abogados y los profesionales y procuradores y por ello espero

y confío en las palabras que aquí se han dicho por parte del partido que apoya el gobierno

gracias de nuevo señora presidenta buenos días de nuevo señorías voy a ver si consigo explicarme con claridad durante todo

la promulgación del decreto del noventa y seis las condiciones en las que se pagaban

fundamentalmente la administración daba unas cantidades de dinero que gestionaban directamente los colegios porque los servicios de orientación las comisiones de los propios colegios decidían

de lo que se trata fundamentalmente con la redacción del decreto es que la administración en tanto que administración pública

que va a ser un servicio obviamente público que se va a pagar con el dinero de todos el dinero de todos aparte con independencia de lo que los colegiados paguemos

tiene que ser claro nítido transparente muchas de las cantidades que se pagaban por el concepto de justicia gratuita iban a parar directamente a gasto estructural

adjudicación de los turnos de oficio por lo tanto de lo que se trata fundamentalmente con el decreto era garantizar que las cantidades de justicia gratuita iban

qué se ha hecho y eso es algo que usted no me podrá negar porque hasta la promulgación del decreto ha habido muchísimas veces en las que muchísimos abogados hemos tenido que acudir

bien lo que fuera bien por juras porque había designaciones de turno de oficio que no estaban cubiertos por el beneficio

y antes pretender como dice el representante de bildu

un ejercicio de inspección fiscal es una perogrullada porque la administración tiene su

vía para acudir a la inspección fiscal pero lo que sí es cierto es que

de manera voluntaria tienen que trabajar siempre con la declaración de ese beneficio y efectivamente

de una manera que no era clara es decir si la ley dice

para el reconocimiento del beneficio hay muchas veces ahora como antes en que los imputados por ejemplo en el ámbito penal no tramitaban la justicia gratuita antes efectivamente todo lo que era vía penal

sin reconocimiento se modificó en situaciones puntuales en los que obviamente se puede prever que las personas afectadas

no van a ser ciudadanos que vayan a tener problemas

estamos hablando de asuntos de tráfico por ejemplo el ejemplo que le puse el otro día es razonable tiene que pagar la administración con el dinero de todos

en un procedimiento abreviado por alcoholemia

porque no les sale del moño hacer la tramitación de la justicia gratuita tiene que pagar directamente la administración eso

de hecho muchas veces las resoluciones de los servicios de orientación jurídica

el archivo de las actuaciones por falta de presentación y se han

qué pasa con los fallidos los fallidos la propia oficina

no se pueden abonar por ese sistema habrá otra vía probablemente una subvención

para sufragar esas posibles situaciones en las que el beneficiario no lo es porque no tiene reconocido el derecho y por lo tanto no lo es hablaba el señor representante de bildu de las aplicaciones informáticas que permiten que una administración se conecte con otra rápidamente y que por lo tanto

efectivamente que no hay ningún problema el problema es que las aplicaciones informáticas

y así de hecho me parece que solo álava la única que tiene el aplicativo informático que facilitaba el gobierno para hacer

en cualquier caso porque se me acaba el tiempo cualquier cosa que cualquier gobierno de este país haga

gestionar los servicios de conformidad con las normas reguladoras de conformidad con criterios de transparencia y de absoluto control será bienvenido no sé

por eso nos vamos a abstener porque no sabemos cómo se va a poder gestionar algo que no es

en cualquier caso repito siempre que las actuaciones de un gobierno vayan en ese sentido nos tendrán de su lado

esaten du existe voluntad de reformar el decreto sin embargo en la transaccional nada se habla de esto

corregirlo en actuación conjunta con los colegios las y los abogados de los colegios no reclaman una etérea declaración de principios no quieren una palmada en la espalda y una promesa de buena

de buena voluntad los colegios y los y las letradas necesitan saber que ante esta situación insostenible este parlamento está adoptando

sólidas un compromiso además de que tenga además una forma legal que tenga

en términos prácticos los abogados esperan la adopción de un compromiso que envíe un mandato claro y nítido a la consejería de administraciones públicas y justicia

en la transaccional eh bildu veíamos necesario que el compromiso se materializase en un instrumento legal en un decreto ya sea ex novo o ya sea incorporando las bondades que tenía aquel de mil novecientos noventa y seis a la actual

que funcionaban ese era el mandato que debía de salir de este parlamento y que no lo encontramos en esta transacción no la vemos suficiente y por eso

voto va a ser el de la abstención sin embargo no como en el caso del pp una abstención de apoyo sino una abstención critica eskerrik asko